no me obligue a dejar de ser nacionalista le agradezco en todo caso señor maneiro que no haya recurrido como en tantas otras ocasiones hemos escuchado también que ser nacionalista es una enfermedad en cualquier caso no es que lo haya dicho usted yo simplemente lo que diré es

bueno unos podremos ser nacionalistas vascos y así lo reconocemos y agradezco

lo que yo tenga que hacer por renunciar a ello de la misma manera que yo no lo hago para que usted renuncie a ser nacionalista español porque usted es nacionalista español también señor maneiro en cualquier caso no es la primera vez que

me la formuló también como usted ha recordado hace dos semanas en este mismo parlamento en el anterior pleno de control al gobierno

le hablé de bilateralidad efectiva de más soberanía y de soberanía compartida de voz propia en europa de un desarrollo íntegro del autogobierno de la imposibilidad de modificación unilateral del autogobierno vasco de respeto a las decisiones democráticas adoptadas por el parlamento y ratificadas mediante una consulta legal y pactada en aquel momento le sugerí

elkarbizitzarako bake bideak documento base en esta materia junto con ados y las ponencias de dos mil siete y dos mil doce del partido nacionalista vasco

le dije que en estos documentos usted podía encontrar respuesta a todas sus preguntas podía comprobar que no existen contradicciones en nuestros planteamientos sino todo lo contrario una coherencia incontestable el documento citado tiene solo quince folios y como compruebo pregunta tras pregunta interpelación tras interpelación que no lo ha leído

no entero tranquilicémonos le haré un extracto será suficiente para que pueda constatar usted mismo que contamos con una posición clara consecuente

hemos asumido esta responsabilidad señor maneiro por qué la hemos asumido y se lo leo también porque la sociedad vasca nos exige un especial ejercicio de responsabilidad y flexibilidad convicciones claras talento negociador diplomacia y humildad

un contencioso político que ha ido alimentando en nuestra sociedad una profunda insatisfacción colectiva a la que hemos de dar una salida la sociedad vasca nos pide una solución para la euskadi de hoy para la nación vasca del siglo veintiuno un acuerdo abierto

a la voluntad de la sociedad vasca expresada por los mecanismos de las democracias avanzadas y que al mismo tiempo comprenda las realidades supranacionales que nos circundan y con las que debemos interrelacionarnos para construir solidariamente un futuro mejor gure irizpideak ere

eta behin eta berriz aurkeztu egin ditut está escrito señor maneiro aprobado en el año dos mil cinco y posteriores y es de plena actualidad y vigencia

de nuestro proyecto para la presente legislatura tal y como presenté ante esta misma cámara en mi investidura y también en el programa de gobierno y sobre esta base nos comprometimos y seguimos comprometidos en hacer un nuevo esfuerzo de entendimiento y acuerdo señor maneiro sobre esta base afirmábamos y seguimos afirmando responsabilidad de los partidos políticos trabajar para evitar que el debate y el acuerdo puedan ser condicionados por otra cuestión que no sea el legítimo debate entre fuerzas de diferente grado de representación popular de diferentes y diversos sentimientos identitarios y con diferentes proyectos políticos como usted sabe este es el momento en el que nos encontramos en la actualidad y a partir le sigo también leyendo la consulta a la ciudadanía es una exigencia política y democrática siempre que se propone una modificación sustancial del marco de convivencia somos conscientes de que esta consulta democrática debe cumplir una serie de condiciones y también están escritas así

es el procedimiento para asegurar su carácter integrador un buen resultado y su viabilidad en la posterior negociación porque para finalizar le diré que nuestro objetivo ante la consulta consistirá en conseguir una mayor adhesión que la

de mentiroso aunque no ha querido reconocer sí usted señor maneiro no ha querido reconocer decisiones de los fiscales en cuanto a lo que han sido

sí señor maneiro estará en el diario de sesiones usted me ha criticado por supuestas contradicciones

por una vez le pido que reconozca que nuestras afirmaciones con todo lo dicho hasta ahora documentadas absolutamente documentadas y que mis manifestaciones son siempre absolutamente coherentes con aquellos pronunciamientos que en el pasado haya tenido

la sociedad vasca nos sigue ofreciendo su respaldo y confianza para que lo llevemos adelante usted está en su derecho de poder pensar y plantear otra cosa pero

tendrá que admitir que la misma sociedad vasca le está poniendo también a usted en su sitio y esto también es una realidad incuestionable señor maneiro eskerrik asko eskerrik asko

incremento constante de votos tanto en euskadi

de españa yo podría empezar exigiéndole que se centre en lo importante como tantas veces suele decirse en este parlamento que se centre en sacar a los ciudadanos vascos de la crisis económica que se centre en la lucha contra el desempleo

que aparque sus pretensiones soberanistas que no impulsen nuevas fronteras que no favorezca la división o que piense en el interés general

porque a diferencia de un servidor que en absoluto es nacionalista español usted sí es nacionalista y por lo tanto como nacionalista lo que pretende al fin es más soberanía para lograr más ventajas políticas y más privilegios económicos esto es lo que es la base del nacionalismo por lo tanto usted es

de que esto es algo absolutamente reaccionario nosotros tenemos que centrarnos digamos en desmontar sus falacias exigirle que cumpla la ley y

habla de bilateralidad habla de más soberanía aunque no dice exactamente cuánta habla de voz propia en europa habla de

pero tiene usted que comprender que aquí tomaremos las decisiones en base a las competencias que tenemos pero desde aquí no podemos obligar

a modificar la constitución por eso yo le decía a usted que no olvide que usted y su partido político en concreto son minoría para llevar acabo esas reformas y en todo caso ya digo esto de respeto las decisiones democráticas adoptadas por el parlamento será

aquellas en las que tengamos competencias señor lehendakari su coherencia es

su estrategia es el doble juego de toda la vida del partido nacionalista vasco su actitud es el victimismo nacionalista y su proyecto creo que es la independencia la independencia a plazos o más bien quizás sobrevivir del cuento de ser nacionalista que tan bien le ha ido a los nacionalismos

de españa es decir buscar un enemigo exterior y hacer victimismo para finalmente lograr

del partido nacionalista vasco y usted habla de que su propósito es cerrar el contencioso

para el nacionalismo vasco cerrar el contencioso es que el resto de los ciudadanos les demos a ustedes la razón

y esto es lo que usted tiene que comprender usted y

el contencioso vasco se acabará en cuanto ustedes nos den la razón a nosotros y esto a nosotros ciertamente nos parece algo profundamente

queremos cambiarla pero no tenemos la mayoría suficiente para poder hacerlo

lo decidimos todos los ciudadanos españoles y que no olvide que el derecho a decidir corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles esto es lo que usted tiene que comprender

comprende cuáles son estos límites democráticos y legales como para que pueda alcanzarse el proyecto político al que usted aspira y efectivamente nosotros también tenemos nuestro propio modelo reforma constitucional

un estado federal simétrico cooperativo dentro de una europa federal formado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias defender la máxima igualdad dentro del país defender que tengamos y vivamos en un país unido y diverso pero dispuesto a ceder también competencias a europa más igualdad

menos fronteras esto es lo que nosotros defendemos estos son los cambios legales que nosotros proponemos y efectivamente puede que estemos ahora mismo

asumimos este hecho y asumimos también la legalidad vigente y los planteamientos básicos de la democracia eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro me resisto a pensar que es en vano

a pesar de la actitud que usted tiene cuando yo intento responderle de no prestarme atención a lo que yo estoy diciendo quizás de ahí se entienda que usted

a utilizar los mismos tópicos tópicos permanentemente sin haber escuchado lo que es

en cualquier caso señor maneiro tenemos una oportunidad genuina para alcanzar la normalización política y si usted entiende la normalización política por lo que usted defiende

participemos conjuntamente en función de lo que es el grado de representación de lo que cada uno tenemos e intentemos convencer en todo caso

y sabe que el reto colectivo de esta sociedad es alcanzar un nuevo marco de relación con el estado

comenzando desde el referéndum constitucional del año setenta y ocho del siglo pasado

encuesta tras encuesta usted ha constatado este hecho diferencial vasco entiendo que usted trate de obviarlo o de ningunearlo pero lo que no puede hacer es negar la realidad señor maneiro

y ahora pidiera que los representantes legítimos de la sociedad vasca en esta cámara levantarán la mano para confirmar la existencia del hecho diferencial vasco

y es posible incluso que si pidiera que levantasen la mano quienes crean que no existe ese hecho diferencial fuera el único que levantará la mano la cuestión vasca existe señor maneiro y nos corresponde a nosotros y nosotras en esta cámara acordar una salida política tenemos una oportunidad genuina

la oportunidad de articular un nuevo acuerdo político de futuro nuestro planteamiento y objetivo es transparente lo tenemos escrito y por eso mismo se lo leo

señor maneiro proclamar el respeto a los marcos constitucionales o a los marcos institucionales actuales así como la posibilidad real de su modificación

la legitimidad de todas las ideas y proyectos políticos que siendo respetuosos con los derechos humanos sean defendidos por vías democráticas pero este principio

como a las formas de administración político institucional de los vascos porque en democracia todo puede llegar a ser posible esto es cualquier proyecto respetuoso

y los derechos humanos no solo debe poder ser defendido sino que debe ser posible materializarlo

necesario y utilice procedimientos democráticos proponemos un acuerdo que respete el pluralismo de la sociedad vasca y para finalizar

que defina un modelo de convivencia así como un marco de relaciones con el estado en las que haya una bilateralidad efectiva garantías

usted señor maneiro sabe que en euskadi este acuerdo de convivencia

que es posible y le puedo garantizar que voy a seguir haciendo todo lo que esté en mi mano para conseguirlo todo menos negar la evidencia de la realidad

la comisión de empleo políticas sociales y vivienda de este parlamento aprobó una serie de medidas destinadas a modificar los criterios que deben regir en al gestión del parque público de vivienda de alquiler que gestiona alokabide en concreto

se aprobaron seis de los ocho puntos de la enmienda de totalidad que presentó upyd eso fue lo que se aprobó

otra enmienda de transacción pactada entre el partido popular y el partido nacionalista vasco se votaron y se aprobaron esos seis puntos

adaptar la orden del tres de noviembre de dos mil diez y sus respectivos reglamentos a fin de que el precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler se adecue realmente a la bajada sufrida en el precio de mercado adaptar la orden del tres de noviembre de dos mil diez y sus respectivos reglamentos de modo que se garantice

incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad adaptar dicha orden y sus respectivos reglamentos a fin de que la renta sea revisada

al alza o a la baja en función de los ingresos de la unidad convivencial obtenidos en el ejercicio anterior a la fecha de la revisión previendo que cuando se produzca un cambio notable en los ingresos la adaptación de la renta de alquiler se haga en el plazo más breve posible y se aplique desde el momento del cambio de situación adaptar

a la prestación complementaria de vivienda que concede el gobierno vasco adaptar la orden y sus respectivos reglamentos a fin de que los propietarios asuman el pago y finalmente adaptar la orden y sus respectivos reglamentos a fin de establecer mecanismos que permitan a los inquilinos su participación directa

con el fin de reducir consumos que puedan ser innecesarios o reducibles nosotros queríamos saber y conocer la postura

cuáles de ellas ya se están cumpliendo cuáles de ellas se están analizando cuáles de ellas tiene intención el gobierno de que

el acuerdo del parlamento efectivamente instaba al gobierno vasco a impulsar diferentes medidas en la gestión de alokabide en relación al sistema de fijación de la renta el mismo límite de la renta el plazo de revisión de la misma el acceso a la prestación complementaria de vivienda el pago del ibi y la gestión de los gastos de comunidad

haya recordado que efectivamente varias de las medias propuestas por la comisión de empleo y políticas sociales

antes incluso de la aprobación de la proposición no de ley

sobre todo cuando se trata de ayudar a personas que están atravesando dificultades económicas y son vulnerables en concreto antes de la aprobación de la proposición el gobierno vasco ya había puesto en marcha las medidas que dan cumplimiento a los apartados segundo tercero y quinto de la misma

de dos mil trece por parte de la viceconsejera de vivienda sobre la aplicación de medidas excepcionales en el cálculo de las rentas del parque de vivienda gestionado por alokabide para aquellos arrendatarios que se encontraran en circunstancias económicas criticas por causas siempre

el objeto de esta instrucción es reducir la renta a aquellas personas cuyos ingresos se hayan disminuido de manera significativa y permanente como medida excepcional no se tendrán en cuenta los ingresos del ejercicio fiscal cerrado sino que se establecerá

que acrediten las personas arrendatarias desde la fecha de aprobación de la referida instrucción en diciembre de dos mil trece hasta el diez de junio de dos mil catorce se han tramitado un total de cuatrocientos cincuenta y tres solicitudes de rentas especiales de las cuales se han estimado el sesenta por ciento y por territorios el cuarenta y nueve coma veintinueve por ciento en araba

siendo el dato de estimaciones en araba el más bajo de los tres territorios históricos

ochenta y seis porque la renta no superaba el treinta por ciento de los ingresos

a la obligación de reintegrar por incumplimiento de requisitos ayudas o subvenciones treinta y dos porque no habían pasado seis meses desde que se suscribió el contrato cinco por negativa a suscribir un acuerdo de pago relativo a la deuda anterior cuatro por constatación de otros incumplimientos contractuales

y dos por inexactitud falsedad u omisión de los datos en conclusión estamos hablando de doscientos setenta y dos unidades convivenciales

en segundo lugar la instrucción uno barra dos mil catorce de veinticuatro de enero

del departamento de empleo y políticas sociales mediante la aplicación de esta instrucción ninguna renta inicial de las viviendas del parque público de viviendas sobrepasa el treinta por ciento

dicha medida se aplica con carácter universal en aquellos supuestos en los que se constata que la renta calculada conforme a la orden de precios de dos mil diez sobrepase el citado treinta por ciento esta se reduce hasta alcanzar ese porcentaje

en este punto debemos destacar en cifras absolutas que la renta media de alquiler de viviendas libres trimestre del dos mil catorce se sitúa en los ochocientos veintiuno coma siete euros mientras que las de viviendas protegidas en trescientos treinta coma veinte euros

los precios suponen una caída del uno coma ocho por ciento de los precios respecto del primer trimestre de dos mil trece en tercer lugar y siguiendo con las medidas adoptadas por el gobierno vasco el consejo de administración de alokabide acordó el pasado treinta y uno de marzo de dos mil catorce con efecto retroactivo en este caso a enero de dos mil catorce abonar

por lo que ninguna persona inquilina del parque público de viviendas del gobierno vasco abonará el referido impuesto que se imputará a los propietarios de las viviendas esta medida supone

este ejercicio de dos mil catorce y también en posteriores ejercicios

lo que supone un nuevo esfuerzo en el ya ajustado presupuesto de la sociedad pública pero que desde el gobierno vasco hemos adoptado al entender que los inquilinos del parque público no deben hacer frente a este impuesto en resumen

el gobierno vasco ya había puesto en marcha con la celeridad que requiere la situación económica y social de muchas familias las medidas a nuestro juicio más importantes urgentes

al resto de las propuestas la valoración del precio de la vivienda el acceso a la prestación complementaria de vivienda y la relativa a los gastos comunitarios en estos momentos en la actualidad

o incluso como en el caso de la prestación complementaria de vivienda en el proceso de debate sobre la futura ley de vivienda debate

surgirá ese nuevo modelo que todos esperamos en todo caso con respecto a la prestación complementaria de vivienda y a los adjudicatarios de viviendas sociales en régimen de alquiler social debiéramos tener en cuenta que

de lo establecido en la proposición no de ley estaríamos concediendo una doble ayuda a determinadas familias y seguramente dejando sin ayuda a otras familias es una reflexión de carácter económico y también de carácter social llevar a cabo por ello le reitero señor maneiro nuestro compromiso para poner en marcha todas aquellas medidas que permitan mejorar en la medida de lo posible la situación de las personas inquilinas del parque público de vivienda es decir la situación de más de seis mil familias y es en este momento donde quiero

con respecto a una posible denuncia por prevaricación a la viceconsejera de vivienda precisamente por incumplimiento de la proposición no de ley aparte

el reproche que requiere en todo caso es un reproche político y no de carácter nunca jurídico el recorrido de esa denuncia será el que tenga que ser pero quisiera en esta cámara en sede parlamentaria y en el entorno de este mostrar mi solidaridad absoluta con covadonga solaguren de la que no tengo duda de su profesionalidad

sí muchas gracias señor consejero muy amable en su respuesta agradecimiento por su respuesta y por la información que nos ha trasladado efectivamente

en esta comisión del día siete de abril que podemos considerar que están ya aceptadas y puestas en marcha por parte del gobierno vasco y efectivamente así lo reconocemos y en concreto la número tres y la

serias dudas en relación a la número dos porque nosotros

pero incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad no sé si esto se cumple o no se cumple o si el gobierno piensa cumplir este asunto o no

únicamente cabe recordarle que es lo que aprobó este parlamento y que por lo tanto el gobierno tiene que tomar en consideración y hacer todo lo posible para que puedan

que lo están pasando mal esperan ciertamente que el gobierno las pueda poner en marcha lo cierto es que en relación a la número uno usted viene a decir que se analizará la posibilidad de que el precio por metro cuadrado

en el precio de mercado claro se analizará es lo que proponía la enmienda firmada por el partido popular y por el partido nacionalista vasco esto es lo que proponía la enmienda

si hay que analizar se analice correcto pero en fin nosotros queríamos tener más información cuando se va a analizar y qué planes tiene en relación a este asunto el

en relación a la propuesta número cuatro cuando se proponía que los inquilinos de alokabide puedan acceder a la prestación complementaria de vivienda que concede el gobierno vasco

gobierno a un grupo parlamentario que esta propuesta el gobierno no la piensa cumplir entonces me gustaría nos lo aclarara es decir si piensa estudiarlo o al menos o analizar esta posibilidad o si efectivamente el gobierno descarta la posibilidad de cumplir el punto cuatro de esa enmienda y lo digo porque lo de analizar la posibilidad de que los inquilinos de alokabide puedan acceder

lo que recogía la enmienda de transacción firmada entre el partido nacionalista vasco y el partido popular es decir propio partido nacionalista vasco proponía analizar

si no me equivoco creo que es así proponía al menos analizar

qué es exactamente lo que hay que analizar y cuándo lo va a analizar y cuándo podría ponerse en marcha

establecer mecanismos que permitan a los inquilinos su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad con el fin de reducir consumos que puedan ser innecesarios

vista también la respuesta que ha dado a uno de los grupos parlamentarios porque

totalmente satisfactorias por lo que puede no ser conveniente la participación de las personas adjudicatarias nosotros también queríamos más información en relación a esta cuestión por qué qué problemas hubo qué problemas observa en relación a esta cuestión también señala el gobierno que se analizará el modelo actual de gestión de los gastos de comunidad en fin cómo cuándo

se podrían poner en marcha en fin los ciudadanos afectados por este asunto están preocupados quieren saber qué es lo que propone el gobierno vasco más allá de que se pueda y podamos reconocer sin ningún tipo de problema que algunas cosas evidentemente

quieren saber quieren saber qué es lo que va a hacer el gobierno y cuándo nos mandaron una carta a cada uno de los grupos nos pidieron que preguntáramos al gobierno y nosotros es lo que hemos hecho analizaremos lógicamente de manera rigurosa su respuesta y a partir de ahí

una moción para que se lleve a buen puerto esta enmienda que ya se aprobó en este parlamento gracias

hasta ahora le he trasladado lo que hemos hecho hasta este momento y ahora le voy a trasladar lo que

como saben en diciembre de dos mil trece se aprobó el plan director de vivienda dos mil trece dos mil dieciséis

al acceso a la vivienda en régimen de alquiler y dentro del mismo se encuentra definida como una de las acciones a realizar el estudio de fijación de precios y de renta así pues el departamento de empleo y políticas sociales tenía contemplada en su planificación para la legislatura

aprobada por el anterior gobierno y en la que no se previeron las medidas que ahora han sido puestas en marcha por el gobierno vasco

sin embargo esta revisión a nuestro juicio necesita de una reflexión sosegada

o no de revisar a la baja los precios máximos establecidos en la misma y en ello estamos en segundo lugar y en relación a la prestación complementaria de vivienda la orden de tres de noviembre del dos mil diez la orden de precios

y como usted sabe en modo alguno establece precepto alguno

en mi intervención anterior le he contado cuál era la reflexión que estábamos llegando a cabo se va a analizar esa situación

dos datos que le recordaba yo hace algún día el cuarenta y uno coma seis por ciento de las rentas de garantía de ingresos

en el estado español se realizan en esta comunidad autónoma es un dato relevante y a mi juicio que nos debe llevar a algún tipo de reflexión

a lo mismo en euskadi y que en el conjunto del estado era del cero coma nueve

para llegar a lo que euskadi está en estos momentos gastando son datos que deben ser motivo de reflexión en último lugar en relación a los gastos de comunidad queremos resaltar que las personas del parque público de vivienda del gobierno vasco abonan estos gastos

en alquiler más importantes de la comunidad autónoma en los edificios de titularidad pública de arrendamientos protegidos las personas usuarias de las viviendas son las que utilizan en su totalidad y de manera exclusiva los elementos comunitarios de los gastos de comunidad existentes los que se repercuten a las personas inquilinas son tres

los suministros comunitarios y los servicios de elementos comunitarios es decir aquellos que están directamente relacionados con el uso que realizan de los elementos comunitarios

cuyos gastos asume en su caso alokabide por ello desde el departamento de empleo y políticas sociales consideramos que debe continuarse con una repercusión a los inquilinos de los gastos de comunidad puesto que la función pública de esos gastos

de las principales entidades públicas garantes del alquiler protegido en la actualidad limitaría el futuro desarrollo y ampliación del parque público de viviendas de alquiler la pregunta es

en conclusión si bien el departamento de empleo y políticas sociales analizará y sin duda revisará también la orden de precios de noviembre

una buena herramienta que está teniendo como efecto la bajada paulatina de las rentas de las viviendas del parque público de vivienda del gobierno vasco como he expuesto en mi intervención inicial

en este año dos mil catorce bajada que será aún más evidente seguramente tras la entrada en vigor de las dos instrucciones

a las que me he referido también en mi intervención anterior para finalizar señor maneiro me gustaría poner en valor una vez más la labor que se viene desarrollando

gestión que se realiza por cierto sin ningún tipo de ánimo de lucro como les gusta expresar a algunos grupos parlamentarios

señor lehendakari miembros del gobierno el pasado

culminando el mapa de la memoria con sugerencias para desarrollar en el ámbito municipal actuaciones de memoria

mientras las víctimas del terrorismo se esfuerzan por seguir reivindicando su papel en la sociedad y realizan importantes estudios como el presentado también ese mismo día

por mezclar a las víctimas del terrorismo con otro tipo de víctimas diluyendo la memoria de aquellas en un conjunto

las víctimas del terrorismo deben tener su sitio específico en nuestra sociedad como en otras sociedades lo tienen o han tenido las víctimas del racismo las víctimas del apartheid y las víctimas del nazismo

qué criterio ha llevado al gobierno vasco a mezclar a las víctimas del terrorismo con otras víctimas en su estrategia de culminar el mapa de la memoria muchas gracias

etiko bat da hori habla usted señor barrio de mezclar víctimas quiere usted decir que debe tratarse de modo diferente a unas víctimas y otras según quién las haya asesinado el documento del gobierno no mezcla víctimas

injustamente asesinadas cumplimos con el principio de igualdad y no discriminación entre víctimas ha sido aprobado por esta cámara en la ley de víctimas y es también el criterio

internacionales de derechos humanos y las propias directivas europeas sobre víctimas este señor barrio es un imperativo ético básico

barrio jauna zurea da hitza gracias señora
presidenta señor lehendakari las mezcla así se titula el documento sugerencias para desarrollar en el ámbito municipal actuaciones de memoria y reconocimiento a las víctimas del terrorismo

por parte de la dirección de víctimas así que sí que hay un cambio estratégico y sí que se mezclan

desde luego algo falla lehendakari algo está mal concebido son dos dimensiones son dos actuaciones distintas igual de importantes las dos seguramente pero no hay que mezclarlas ayer precisamente señor lehendakari hablábamos

confundirlas en ámbitos es lo que hace usted diluirlas usted es

en diluir la memoria de las víctimas del terrorismo ahora quiere llevar a los ayuntamientos esa disolución de la memoria de las víctimas tenía razón el señor txema urkijo

faltaba un gesto relevante con las víctimas del terrorismo

confundir mezclar realidades ese es el gesto del gobierno ayer hablábamos señor lehendakari de rigor histórico en el estudio

también le pedimos rigor histórico en la memoria de las víctimas del terrorismo señor

exigen su identificación y su propio reconocimiento y usted señor lehendakari se esfuerza en mezclar su memoria con otras realidades identificables calificables cuantificables también sí pero

diferentes sociológicamente jurídicamente históricamente usted señor lehendakari utiliza su olvido con las víctimas del terrorismo su disolución en estrategias uniformizadoras y distorsionadoras

teoría del conflicto y eso es una pena señor lehendakari usted cadadía de olvida más de las víctimas de eta y de las víctimas del terrorismo

a una organización terrorista que sigue atentando con su presencia con sus comunicados y hay muchos crímenes de eta sin resolver

si cada iniciativa que se plantee aquí es porque dicen los medios de comunicación como usted ha dicho pues mal vamos mal vamos me entristece y esto se lo digo personalmente también

su falta a la verdad con respecto a lo que es mi compromiso personal e institucional con las víctimas del terrorismo y de la violencia

y se lo digo claramente tener en cuenta a todas las víctimas no significa ni mezclarlas todas las víctimas del terrorismo y de la violencia de abusos policiales no significa ni mezclarlas ni significa compensar unas con otras esto sería éticamente inaceptable tampoco olvidar la especial significación de la violencia de eta que asesinó a ochocientos cincuenta

víctimas en cinco décadas referirse a todas las víctimas significa aceptar que cada familia

asumir que institucionalmente estamos obligados a actuar bajo el principio de igualdad y no discriminación son las propias víctimas las que asumen este principio las propias víctimas y lo aplican en iniciativas que lo están materializando

baita zure taldearen aldeko botoarekin ere tengo la convicción de que usted y su grupo están de acuerdo en situar el principio básico del suelo ético

en las iniciativas municipales de memoria la convicción de que están de acuerdo en promover el consenso para que el día diez de noviembre sea el día de memoria de todas las víctimas en todas las localidades espero

y cuando me pregunta el periodista hablando de política fiscal le consta que haya fuga de empresarios a bizkaia y a araba

que sí me consta que hay empresarios que se están yendo de gipuzkoa a otros territorios por este impuesto

alguno incluso llega a decir que tendría que endeudarse para hacer frente a lo que le pide la haciendo foral y digo más cuando me pregunta le han solicitado ayuda para intentar que se armonice este impuesto en todo euskadi para que se dulcifique en gipuzkoa

concretamente los empresarios piden que se modifique que bildu sea consciente de que este impuesto está haciendo mucho daño a los empresarios que lo único que han hecho ha sido invertir en sus empresas todo lo que han ganado y esa apuesta que hacen por mantener la empresa la riqueza y los empleos en este país ahora se castiga eso no se está entendiendo el cambio de sede de un territorio a otro provoca un desequilibrio importante como país es un desastre

me preocupa porque es malo para el conjunto tenemos que cuidar que las empresas se mantengan

en un desierto eso es lo que digo literalmente señor urruzuno dónde está el apoyo y la justificación a la elusión fiscal

en cuál de estas palabras dice usted que está esa apología lo que sí nos preocupa y sí tenemos preocupación y grande es por lo que se está haciendo en gipuzkoa porque la defensa

por parte de la diputación foral de gipuzkoa y por nosotros y reconocer a esas empresas y empresarios que han estado trabajando que generan empleo y generan riqueza son el uno por ciento sí pero generan empleo para el veintidós por ciento de este país que no es desdeñable por ello

lo que hace este gobierno es acompañar con medidas concretas

y acompañar y reconocer al empresario que realmente invierte en este país y genera empleo y riqueza eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua

consejero la atención a las personas en situación de dependencia es absolutamente necesaria desde el punto de vista de los derechos sociales y del sostenimiento del estado de bienestar en nuestra comunidad autónoma hay cuarenta y dos mil trescientos noventa y uno personas dependientes con una prestación

la ley treinta y nueve barra dos mil seis de promoción de la autonomía personal y atención a las personas es una ley estatal cuya gestión directa corresponde a las comunidades autónomas el gobierno del partido popular lleva años buscando mecanismos para reducir a la mínima expresión

que precisan de estas ayudas para la normalización de su vida diaria

en la ley de dependencia el gobierno vasco no tiene por qué someterse a ese criterio puesto que tenemos competencias exclusivas en servicios sociales señor consejero compartimos la importancia de desarrollar la ley de los servicios sociales el elemento central de esta ley está en la declaración

constituido en un derecho de ciudadanía esto implica la construcción de un sistema vasco de servicios sociales configurado como un sistema de responsabilidad pública y de cobertura universal

la ley define elementos fundamentales el catálogo de prestaciones y servicios la posterior regulación en una cartera de prestaciones y servicios que definiría sus principales características y los requisitos básicos de acceso el diseño impuesta en marcha el funcionamiento de un sistema integral de información

y en concreto el borrador de decreto de cartera de prestaciones y servicios del sistema vasco

la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a las personas cuidadoras no profesionales y contempla los requisitos aplicables a las personas cuidadoras por eso

pueda cobrar la ayuda estipulada en la ley de dependencia sin aplicar la exigencia del gobierno de españa de acreditar un año previo de atención por parte de las personas cuidadoras

sailburu legebiltzarkideok competencias exclusivas sí señora sarasua ya nos hubiera gustado que

al dictar la ley de la dependencia hubiera tenido en cuenta esas competencias exclusivas cuyo juicio de constitucionalidad finalmente no tuvo ocasión y seguramente por determinados pactos que hubo en aquel momento

en todo caso si estamos hoy hablando de este tema aquí es porque alguien ha querido crear una polémica

la aplicación o no de la exigencia de acreditar un año de atención para cobrar la ayuda por cuidados en el entorno familiar

exclusivamente de la voluntad de las diputaciones forales que son quienes pagan el servicio

quienes pagan el servicio el gobierno del estado decidió incluir esta restricción mediante resolución de trece de julio de dos mil doce y recogida luego en el real decreto

que unificaba todos los desarrollos normativos que habían tenido la ley de la dependencia el artículo doce exige que

el cuidador haya convivido y cuidado la persona dependiente durante el periodo previo de un año las diputaciones forales son las que en la práctica

han ejercido su competencia de otra manera sin entender que este año debiera ser de aplicación y han llevado mayoritariamente

en la que no han tenido en cuenta esa situación en consecuencia por esa actuación dejaron de percibir por ese año la parte de financiación que correspondía a la administración del estado en

cuando se introdujo cuando introdujimos desde el gobierno esa referencia en uno de los borradores de trabajo de la cartera de servicios sociales no se hizo

porque sabíamos que las diputaciones seguirían con su mismo modelo de gestión y que no afectaría en nada a las personas demandantes del servicio si se introdujo

normativa pero no la ejecutiva sobre las prestaciones y servicios que no era el gobierno

la atención de estas situaciones desde el primer día sobre todo porque había algunos casos que usted conoce bien en los cuales se venía aplicando ese año

era un acto voluntario de las diputaciones forales si las diputaciones mayoritariamente no quieren que aparezca esa referencia se elimina

nunca lo ha habido sobre todo porque la decisión última sobre como actuar ha estado y está en manos de las diputaciones eskerrik asko

sí señor consejero usted dice que depende de la voluntad de las diputaciones pero usted ha dicho en varias ocasiones que las prestaciones para cuidados en el entorno familiar en estos tiempos de crisis están sirviendo para atender a las personas mayores para servir de soporte a las necesidades básicas de las familias por ello

antes de obtener el reconocimiento económico a su situación se les exija pasar un año cuidando a su familiar con dependencia la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres señor consejero y son precisamente las mujeres

por las distintas medidas adoptadas por el gobierno del partido popular la ley de los servicios sociales persigue reconocer derechos homogeneizar igualar a los ciudadanos y ciudadanas construir el sistema de servicios sociales vasco pero no se trata de igualar por abajo

de personas a ciertos servicios ni de dar rango de suficiencia a los servicios

no se trata de retroceder en derechos los socialistas no aceptaremos que se aplique la exigencia del gobierno de españa de acreditar un año previo de atención por parte de las personas cuidadoras el desarrollo de la ley es importante para garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos y seguiremos intentando llegar a acuerdos para que estos

no ha habido recorte de derechos ni intención de recorte de los mismos se quita y ya está

hacerlo de conformidad con las diputaciones así lo vamos a hacer en todo caso me preocupa que se realice este debate sobre las prestaciones económicas

sobre las prestaciones que son los servicios los que generan empleo y no las prestaciones que son los servicios los que generan cuidados y sin embargo estamos fomentando también con esta prestación estamos fomentando las prestaciones

gracias presidenta señor consejero

si van a cumplir o no con el mandato del trece de febrero no necesitaría circunloquios y entiendo que la respuesta tampoco pero la pregunta tiene alguna explicación

es por qué el gobierno no ha creado todavía el marco administrativo para la calificación y registro de los centros especiales de empleo de acuerdo con el mandato del parlamento vasco claro el veinte de mayo el gobierno aprobó una línea de ayudas de diez millónes de euros de las cuales una de ellas iba para discapacitados a las que se podían acoger como entidades beneficiarias los centro especiales de empleo

este mandato lo que decía era que se habilitará y se creará dicho registro cosa que no han hecho esa línea de ayudas se aprueba por una resolución que se pública en el boletín del país vasco el veintidós de mayo y se da un plazo de un mes o sea en nueve días se acaba ese plazo los centros especiales de empleo

aquellas iniciativas de base social que quieren traducirse en centros especiales de empleo no pueden acogerse a esas ayudas no les da tiempo material por eso la pregunta por qué

faltando ya escasos días para que acabe el periodo de sesiones eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok señor itxaso la razón de que dicho administrativo no esté aún creado es tal y como en su momento también advertimos que el tiempo requerido para ello si se quiere hacer

es mayor que el establecido por el acuerdo al que hace referencia como ya explicamos en su día en la comisión parlamentaria nuestro objetivo era elaborar

para el conjunto de las políticas de apoyo al empleo de las personas con discapacidad y en ese marco jurídico propio establecer la normativa

al cual su pregunta hace referencia este planteamiento

y tuvimos que reorientar el trabajo a diseñar la creación del registro de centros especiales de empleo sin un marco jurídico cierto lo que a nuestro entender dificulta la tarea a pesar de esa dificultad en estos momentos disponemos de un borrador de decreto que necesita más trabajado y cuyo proceso de contraste con los propios agentes sociales ya ha comentado pero a día de hoy ya hay un borrador de ese futuro decreto

este año que era lo que nosotros proponíamos en aquel momento

cuestiones que no se resuelven de la noche a la mañana y que están relacionadas también con marcos financieros teniendo en cuenta señor itxaso que representa usted a un partido socialista y de euskadi estoy seguro que no le dará lo mismo que las empresas que aspiran a financiación del gobierno vasco para promocionar el empleo de personas con discapacidad sean sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro estoy seguro que también será relevante para usted que sean empresas de iniciativa vasca

para beneficiarse de esa financiación para nosotros no es lo mismo y no nos vamos a precipitar eskerrik asko aburto jauna

señor consejero no sé porqué introduce este elemento sobre si empresas de fuera o de aquí el registro

en lanbide porque tenemos competencia para ello yo en su día ya le dije existen comunidades autónomas que no tenían vocación de serlo que ya en su momento habilitaron esos registros y le diré la comunidad de madrid tiene un decreto el noventa y seis barra noventa y siete de ocho artículos y tres disposiciones

tiene creado el registro con once artículos y cuatro disposiciones la de canarias cinco artículos si es que realmente eso no es complicado eso no es complicado en este momento lo que está ocurriendo es que además de no cumplir con el acuerdo de este parlamento aquellas iniciativas que querían transformarse en centro especiales de empleo y acogerse a las ayudas de dos mil catorce

yo señor consejero de verdad debo decirle que cuando aquí se adopta un acuerdo contra la voluntad del gobierno y del partido que lo sustenta ustedes muestran signos de contrariedad como si realmente se vieran compelidos a tener que cumplir algo que no les gusta si al final no lo cumplen

ustedes realmente su compromiso con las personas es muy selectivo con unas sí o con otras no

tanta tarea ni tanto trabajo si tienen digamos un horizonte o un plan

se pueden habilitar esos tres instrumentos para que efectivamente dentro de lo que son las políticas activas de empleo

en asociaciones fundaciones y que se quieren transformar en centros especiales de empleo y acogerse a las ayudas correspondientes puedan hacerlo y ustedes no lo están permitiendo

en fin yo creo que ustedes por otra parte también están demostrando que a las instituciones solo las respetan

los mismos aires que ustedes es decir si no las controlan o no las gobiernan ya no respetan tanto porque es que aquí se adoptan acuerdos que ustedes luego al final

podrán ser atendibles o no pero no son de fuerza mayor esos registros se podían haber creado y en estos momentos habría ya iniciativas que solicitarían dicha inscripción y podrían acogerse a dichas ayudas por lo tanto usted me está diciendo aquellas que están en espera este año no van a poder acogerse a las ayudas porque los plazos que han dado por lo menos para esta línea de ayudas ya no va a poder ser eso es lo que me está diciendo no van a cumplir ni siquiera en el periodo de sesiones habilitar ese registro y por supuesto la otra cuestión que era darle un carácter retroactivo al uno de enero tampoco porque los plazos para la solicitud se acaban creo que eso es en fin un juego

un poco sucio es decir hay gente que esta pidiendo eskerrik asko itxaso jauna amaitu da denbora

yo le pediría señor itxaso que reflexione brevemente sobre dos cosas que ha dicho juego sucio y trato discriminatorio en función de que

le pediría que lo reflexione y que tras la reflexión que lo retire

sabe usted que no es cierto no hemos cumplido pero la razón no es la que usted ha manifestado está fuera de toda duda nuestro compromiso con el empleo

y como lo ha estado el de todos los gobiernos anteriores tanto en lo que al mantenimiento de puestos de trabajo se refiere como a su mejora y crecimiento hemos hecho el grueso del trabajo en estos cuatro meses no hemos estado ociosos se han estudiado distintos modelos de registros existentes en la actualidad el registro no es solo un registro de tres o cuatro artículos

mucho más importantes que el simple hecho de estar registrado se elaboró un primer estudio y como resultado del mismo tenemos un borrador de decreto en estos momentos no nos vamos a precipitar porque hay cuestiones cruciales que determinar

que una sin ánimo de lucro operando en el mundo del trabajo de las personas con discapacidad y usted lo sabe nosotros queremos un marco administrativo y en ello estamos empeñados

los requisitos para obtener la calificación el inicio del procedimiento

la subsanación de la misma la competencia la resolución el libro de inscripción el seguimiento y el control la descalificación y calificación registral disposición adicional primera sobre la utilización de los medios electrónicos en el procedimiento disposición adicional sobre tratamiento de datos disposición transitoria

señor consejero hemos querido traer este asunto a debate porque nos parece ciertamente un asunto muy importante que hay que

entre todos se trata de la siniestralidad laboral el país vasco tiene uno de los mayores índices de siniestralidad laboral en españa

trabajadores los diferentes estudios que analizan esta materia

desde la primera posición hasta la quinta entre todas las comunidades autónomas estos datos son a todas luces inadmisibles esta es otra que no coinciden tampoco unos datos con otros no coinciden los datos del gobierno vasco con los datos de osalan con los datos de los sindicatos

y no entendemos por qué no coinciden y hay quien dice incluso que los datos se maquillan en todo caso los datos son los que son y es evidente que nos encontramos ante un problema que hay que resolver un

pero que evidentemente se puede y se debe resolver

dirá que los accidentes en cifras absolutas han descendido en los últimos años pero además de decirle que siguen siendo demasiados obviamente hay un

en función del número total de trabajadores y esa cifra nos da que sí aumentan los accidentes en concreto un cero coma siete por ciento respecto a dos mil doce hay datos que son por lo tanto muy preocupantes datos que han sido publicados en la página de osalan

con los cuatro primeros meses de dos mil trece pero han aumentado los accidentes graves nada menos que un treinta por ciento y se mantiene la misma cifra de accidentes mortales en los dos años en esos cuatro primeros meses de cada año la pregunta es qué medidas está adoptando su departamento para conseguir reducir

usted hace algunos días decía que queda trabajo por delante estamos de acuerdo con esto se trata de sacar adelante ese trabajo gracias

bai mahaiburu andrea legebiltzarkideok señor maneiro los datos de osalan y del gobierno coinciden se lo aseguro los datos de las consultoras

hay muchas fuentes algunas son simples explotaciones estadísticas otras oficiales que utilizan criterios diferentes que presentan datos dispares sobre la incidencia de la siniestralidad laboral en el conjunto del estado es cierto que en alguno de estos informes euskadi no figura en conjunto entre los mejores pero la perspectiva es diferente si se analizan con un cierto

del ministerio de empleo y seguridad social de fecha de marzo de dos mil catorce euskadi es una de las comunidades

de la misma manera es detrás de cataluña la comunidad con menor índice de incidencia de accidentes graves son datos relevantes los dos

por lo tanto vamos a apuntar que ese dato al que usted hace referencia

leves qué nos sitúa por tanto en conjunto en esa parte baja de la tabla pues eso los accidentes de carácter leve cuál es la razón de esto

una actividad en la que la incidencia de accidentes es mayor por otro lado también el esfuerzo que desde hace años se realiza en osalan por aflorar todos y cada uno de los casos que de otra manera quedarían ocultos a la estadística

y lo que es más importante quedarían ocultos también a las medidas de prevención que se podrían realizar de esta manera se procura recabar de forma exhaustiva todos los accidentes consideramos que el buen trabajo realizado en este caso

queda patente por la constante reducción de los diversos índices de incidencia de los accidentes laborales en euskadi desde el año dos mil desde el año dos mil

viene bajando y la mejor garantía de mejora de esos índices

brevemente señor consejero gracias por su respuesta yo espero que los datos reales sean los mejores datos posibles y que efectivamente año a año sean mejores creo que hay que reconocer que tenemos un problema un problema que está ahí y que lógicamente hay que hacerle frente y a partir de ahí tomar todas las medidas necesarias para por eso yo le preguntaba por medidas concretas que vaya a impulsar o poner en marcha este gobierno de aquí en adelante puesto que hace escasos días usted decía con acierto que queda

efectivamente hay muchísimos factores que influyen en este asunto el tipo de trabajo la experiencia laboral el sector del que hablemos en el caso de euskadi

también tiene incidencia incidencia negativa la reforma laboral entiendo yo la temporalidad o la precariedad laboral que inciden negativamente

tiene que haber un mayor control tiene que haber una mejor formación creo que hay que reforzar el sistema de inspección de trabajo

técnicos y presupuestarios creo también que hay que obligar a las empresas a que cumplan la ley y algo que me parece muy importante concienciar a los trabajadores

cuáles son sus derechos y sus obligaciones esto como poco y seguramente

le insisto que euskadi es una de las comunidades del estado con menor número de accidentes mortales y graves yo creo que ese dato es muy importante muy importante también los datos

los datos no se maquillan los datos se dan de manera fehaciente con absoluta transparencia los datos parciales y generales sobre accidentes mortales graves leves y también sobre enfermedades profesionales no hacen sino descender año tras año en el dos mil trece las empresas contabilizaron

en jornada laboral lo que supone un descenso del tres coma nueve por ciento

se redujo en un trece coma ocho por ciento en términos absolutos y en un diez por ciento si miramos el índice que refleja los accidentes mortales por cada mil trabajadores que es un dato que no tiene nada que ver con la actividad económica

se redujeron en un tres coma cinco por ciento y con respecto a la mejora de las actuaciones en esta materia por parte de osalan es cierto que yo dije que hay que analizar

que ya se han puesto en marcha y se está elaborando la futura estrategia del gobierno vasco dos mil quince dos mil dieciocho en materia de salud y seguridad en el trabajo

legebiltzarkideok sailburua el consejero de empleo y políticas sociales en la presentación del plan estratégico de lanbide y al analizar la situación del servicio vasco de empleo reconoció que no se presta un servicio de calidad y que debe de introducirse cambios para mejorar concretamente lo que respecta la intermediación laboral en relación a la tasa de intermediación laboral de lanbide

registrados representa el dos coma uno por ciento esas cifras están muy lejos de los objetivos a alcanzar y de lo que se espera del servicio

para que lanbide servicio vasco de empleo sea de alguna utilidad en la intermediación laboral

cada vez que he tenido una comparecencia pública para hablar de lanbide he hecho de forma sistemática dos cosas explicar aquello que a nuestro juicio y al de la mayoría de la sociedad no funciona bien en lanbide como un ejercicio

e inmediatamente después explicar las mejoras ya introducidas

estamos aplicando es bueno estar sobre aviso de las dos cuestiones que yo planteo lo hemos hecho en esta cámara

la última el nueve de mayo en comisión cuando como usted ha reconocido explique el plan estratégico de lanbide de todo ello solo recogió usted lo que dije sobre lo que no nos gusta del funcionamiento de lanbide pero veo que todo el resto todo el plan estratégico todas las medidas que hemos aplicado y que queremos aplicar

público vasco de empleo se le escaparon en cierta medida no dispongo de mucho tiempo por eso me limitaré a recordarles que el plan de lanbide

tres ejes estratégicos de proceso que se desarrollan en veintitrés objetivos y a su vez estos en cincuenta y ocho líneas de acción

se han definido ya para este año dos mil catorce más de doscientos acciones concretadas en el plan de gestión anual dos mil catorce para hacer realidad esa transformación

y concreto más citándole alguna acción de esas doscientos para el año dos mil catorce primera realizar un proyecto piloto de intervención integral en el ámbito local intervención integral que abarque intermediación formación y empresas segundo implantar procedimientos y herramientas para que las empresas

en tercer lugar diseñar un sistema que permita conocer el grado de ajuste de los perfiles de las candidaturas enviadas a los requisitos de los puestos de trabajos ofrecidos en cuarto lugar

mayor valor añadido a la oferta de servicios a personas y empresas en intermediación laboral hablé además de centrar la labor de los directores de las oficinas de lanbide en la intermediación de acuerdo con las patronales para promocionar la participación de lanbide

de todo esto también hablamos en la comisión eskerrik asko aburto jauna garrido andrea zurea da hitza

fijamos en una de las funciones esenciales de lanbide tal y como está estipulada en la ley correspondiente y es la intermediación y las

de otras comunidades autónomas peor que en otras comunidades autónomas incluso peor que la media

las políticas por lo tanto estas son las cifras y esta es la realidad y nos fijamos en lo que realmente dice la ley que es el objetivo y uno de los fines y la finalidad de lanbide servicio vasco de empleo y estamos muy lejos de cumplir ese objetivo fijado por la ley la cifra por lo tanto es claramente preocupante y pone de manifiesto

es así señor consejero y la transferencia de las políticas activas de empleo y la creación de lanbide en el año dos mil once constituían una oportunidad para conectar las prestaciones económicas previstas en la ley y la empleabilidad y le vuelvo a repetir

en materia de intermediación los resultados no son para nada positivos y están muy lejos de los objetivos que se marcaron

nos preocupa las políticas de empleo nos preocupa que no sean una auténtica prioridad para este gobierno y deberían de ser la auténtica prioridad de este gobierno

estratégico de empleo tiene un horizonte de dos mil dieciséis

para mejorar la intermediación de lanbide recientemente en el debate del plan estratégico

una guía con propuestas concretas para llevar a cabo propuestas como proporcionar

a las necesidades del mercado de trabajo que haga real y efectiva la colocación de los desempleados mejorar la eficacia y eficiencia de lanbide para hacer real y efectivo

materializar las ofertas de empleo de manera inmediata mediante un procedimiento de calidad que permita resultados eficaces en la intermediación entre empleadores y demandantes de empleo

absolutamente ridículo y está muy lejos de los que deberían de ser para que realmente lanbide como le decía cumpla

en definitiva que lanbide sea un verdadero y auténtico referente en la intermediación que es lo que tiene que ser y para ello hay que tomar medidas que mejoren la eficacia y eficiencia de lanbide en la intermediación

desempleadas por eso señor consejero le instamos al margen de que ya sabemos que tuvimos un debate específico sobre esta cuestión para que adopte medidas de forma inmediata y urgente para mejorar esas cifras que están muy lejos de lo que debería ser la intermediación del servicio

con esta pregunta es utilizar mi ejercicio de transparencia y de honestidad en lo que es el reconocimiento de lo que no funciona bien como base para

objetivos de intermediación en lanbide hasta ahora nunca por primera vez sí

por primera vez hay un plan estratégico y las medidas a las que usted ha hecho referencia la gran mayoría están en los cuatro puntos le he leído la mayoría están en esos cuatro puntos señora garrido por lo tanto permítame que la hoja de ruta del partido popular sea una más

en todo caso no estamos satisfechos una vez más se lo digo para que lo pueda seguir utilizando no estamos satisfechos con los niveles de calidad de lanbide pero estamos por encima de la media del estado no se utiliza ese dato estamos por encima queremos más y estamos convencidos de que todas las personas que trabajen en lanbide

heredamos un sistema de intermediación absolutamente ineficaz y nos hemos comprometido en sede parlamentaria a mejorar esa eficacia en más de un cien por ciento
heredamos también la gestión de la rgi eskerrik asko aburto jauna

hilabete luze bat izan arte ez dago erantzunik señor consejero la situación se vuelve a repetir si en mayo usted reaccionó a escasas horas de la convocatoria de prensa por parte de la diputación de gipuzkoa mandando una respuesta hoy

y ante la interpelación que desde euskal herria bildu le hacíamos vista la inacción del gobierno en la formación de la comisión

reacciona una vez más a escasas horas lo que nos queda claro es que actúan solamente

y eso ha quedado hoy claro porque la secuencia es muy clara señor consejero en enero ante la convocatoria de la comisión mixta que usted me dice que tuvo información usted sabe tan bien como yo que usted fue a las diputaciones forales cuando usted tenía en acuerdo cerrado con el estado español y a partir de ahí les dijo y porque todos eran responsables fueran y se firmó y usted sabe que hubo

que no les había parecido correcto y se le comentó a usted esta situación de poder hacer algo para poder trabajar en conjunto

de fuerza y para ir con verdadera fuerza a las negociaciones con el estado en febrero la diputación de gipuzkoa presentó oficialmente en el consejo vasco de finanzas un documentos en el que decía que quería esta comisión

qué propuestas había y en esa misma comisión ustedes hablaron y usted dijo que en quince días se comprometía a trabajar sobre ese tema y a hacer una propuesta consensuada

que por diferentes motivos de trabajo se retrasó en su propuesta así fue en abril yo le pregunté y fue cuando me dijo que esa propuesta había llegado estamos ya en abril en mayo

una rueda de prensa para dar información a la sociedad de en qué fase está la creación de esta comisión

usted aparentemente reacciona y da una respuesta ahora en junio desde euskal herria bildu le ponemos esta para saber qué temas se van a tratar que espero que me lo explique en su siguiente intervención usted reacciona otra vez y esta semana

sobre la comisión usted vuelve a contestar pues me parece muy bien pero evidentemente gu argi dugu gu gai honekin tinko jarraituko dugu

muchas gracias señora presidenta señora uriarte

meses tratando de desviar la atención pública tratando de enredarnos a todos en debates sobre lo que hacen los demás veíamos esta mañana

desvíen el foco de la actualidad educativa en el país vasco sobre lo que ocurre fuera de nuestra comunidad y en cambio así poder evitar que se hable de los problemas que tiene la educación vasca y la pobre gestión

vasca pero mientras tanto queremos traer aquí un asunto concreto educación obliga a que las clases

doce alumnos para reducir gastos centros profesores y sindicatos censuran que la nueva regulación de esta etapa dejarán a decenas de docentes sustitutos sin trabajo los directores de educación

adultas amenazan por dimitir por lo recortes bien señora consejera los centros de educación de personas adultas los son la última oportunidad para muchos colectivos de reengancharse al mercado laboral

de oferta permanente responde a las necesidades de quienes encontrándose en situación de desempleo buscan formarse actualizar y mejorar su formación obtener algún tipo de titulación que facilite su futuro acceso a un puesto de trabajo también de quienes precisan

aquellos centros a los que acuden quienes tratan de conseguir titulación de la eso porque abandonaron sus estudios un certificado un diploma que acredite una formación básica

preparar el acceso a ciclos superiores de formación profesional o a la universidad o de quienes simplemente buscan en

un enriquecimiento también personal cultural etcétera

del español para inmigrantes es desde hace una década uno

más demandados en los centros de epa caben

incorporan la oferta de informática de inglés de historia

de habilidades sociales etcétera hablamos de una treintena de centros en nuestra comunidad

y con cientos de profesores que están esperando respuestas por parte de su departamento llenos de incertidumbre a partir del mes de mayo el quince de mayo su departamento publica una resolución que pretende regular la configuración de grupos y la relación de puestos de trabajo en los centros de educación de personas adultas en dicha regulación se han establecido números mínimos como le decía

para configurar grupos y se limitan los grupos de enseñanza no reglada estudios para el aprendizaje del euskera del castellano para los inmigrantes como decía para la preparación de acceso a la universidad a los ciclos

a los certificados de profesionalidad etcétera al tiempo que se reducen

sus nuevas previsiones la oferta de enseñanza reglada con la nueva normativa el departamento de educación cambia los criterios

para así poder justificar el recorte en la dotación

es decir que en la enseñanza reglada al cambiar los criterios para la configuración de grupos

de manera directa y en la enseñanza no reglada al no poder haber más grupos que en la reglada porque eso dice la norma se añaden nuevas restricciones dejando de ese modo sin posibilidades de estudio a esas personas

especialmente este momento para poder formarse adecuar su formación para poder reingresar en el mercado laboral en algunos casos

que me refería en los grupos de castellano de español para emigrantes

sufrir recortes de hasta un cincuenta por ciento en muchos centros de nuestra comunidad por

lo que nos parece muy grave a los profesores que se ocupan de los alumnos con necesidades educativas especiales lo que supondría la salida de los estudiantes de esos centros esos estudiantes los que más lo necesitan los estudiantes con necesidades especiales y suprimen a los profesores de refuerzo que atienden específicamente a quien más lo necesita

en los grupos de castellano para inmigrantes a cuatro les reducen a cuatro horas cuando hasta ahora eran seis horas

según los cálculos de los propios sindicatos una disminución de casi el cuarenta por ciento de la plantilla en los centros

parece ser que la respuesta que hemos escuchado por parte del departamento en las últimas fechas es que aplicará

no es reducir la plantilla seguramente va a salir usted a decirnos que

las directrices que usted fija a partir de esas resoluciones de mayo lo que conducen

a la reducción de la plantilla a expulsar a trabajadores de esos centros y a reducir las posibilidades de que

que quedarán fuera a partir del próximo curso desde luego unas decisiones que no cuentan con el respaldo de la comunidad escolar

desde luego que no ha sido sometida a un análisis desde luego concienzudo que desde luego no ha habido diálogo con el sector y en todo caso

con las nuevas exigencias para montar una clase habrá menos grupos de los que hay este curso por si fuera poco se adelanta

era septiembre y resulta que ahora con esta nueva norma de repente se pasa a junio

de junio qué va a ocurrir cuando los alumnos vengan a matricularse en esos centros

a los alumnos que se quedan fuera que se quedan en la calle qué no hay sitio cuándo siempre lo ha habido que recortan que han decidido no prestar atención a los centros de enseñanza para adultos que la ley que aprobamos aquí

qu era papel mojado que se queda en el cajón que este gobierno

de reforzar de mantener al menos la oferta educativa para adultos en nuestra comunidad desde luego esta decisión adoptada por

ya que desde luego antepone los criterios de ahorro en personal en recursos a la cobertura de un derecho

para todos una decisión que pone en peligro el derecho fundamental a la educación destruye puestos de trabajo y además

que en este momento están prestando un servicio y hacen

me gustaría que además venga aquí a explicarnos por qué han decidido poner trabas a las personas con necesidades especiales a aquellas que necesitan más apoyo en este momento qué les van a decir a las familias

a cientos de personas inmigrantes que necesitaban como formación básica las enseñanzas en castellano y que no tienen acceso a las escuelas de idiomas me gustaría que nos cuente exactamente

hay muchísima gente que en este momento depende de esas decisiones

por cierto al igual que se realiza en la totalidad de los centros educativos de cualquier nivel de enseñanza con el fin de ajustar su oferta a la demanda real es decir hemos preguntado a los propios centros cuál es la matrícula de que disponen para poder asignar los recursos adecuados a la misma el veinte de junio de dos mil trece junto con las instrucciones previas al comienzo de curso se indica a los centros que se establecen dos períodos de matrícula

para facilitar este proceso de matrícula y conocer el funcionamiento y diseño de la aplicación informática la dirección de centros organizó una sesión formativa el día tres de julio de once trece cero en el salón de actos de la sede del gobierno vasco y esto es un punto muy importante porque es la primera vez

asimismo resulta necesario establecer unos criterios de configuración de grupos y asignación de los necesarios recursos humanos a través de la correspondiente resolución a fin de contrastar el contenido de dicho documento con los propios centros y sindicatos la dirección de centros les remite este documento en fase de borrador

cabe indicar que varios centros y un sindicato presentaron alegaciones a dicho documento todas las alegaciones presentadas fueron analizadas algunas de estas se desestimaron mientras que otras fueron admitidas

quisiera recalcar que hasta el momento la rpt se hacía sin criterios generales a través de las delegaciones esto ocasionaba unas diferencias de tratamiento de un centro a otro

las relaciones de puestos de trabajo deben elaborarse con criterios comunes para todos los centros al igual que se hace con la totalidad de los centros de los distintos niveles educativos del sistema

se publica por primera vez la resolución de la dirección de centros por la que se regulan los criterios de configuración de grupos y la elaboración de la rpt para el curso dos mil catorce dos mil quince

como tal por primera vez el contenido de la misma así como los criterios en ella establecidos son los mismos que venían siendo recogidos en los cursos anteriores en las resoluciones de la organización de los centros es decir no hay gran cosa nueva de hecho no se han variado

a excepción de una modificación llevada a cabo precisamente como consecuencia de una de las alegaciones presentadas concretamente se ha accedido a rebajar rebajar estoy diciendo de diecisiete a doce el alumnado mínimo exigido para formar el grupo en el grado uno en definitiva estos son los criterios establecidos en la citada resolución

tras analizar las alegaciones se les envía una nueva propuesta de rpt

admitiendo una segunda revisión en algunos casos concretos en definitiva podemos concluir lo siguiente se ha realizado un ejercicio de responsabilidad que he permitido una adecuación de la rpt a las necesidades reales de los centros de educación de personas adultas por primera vez

atendiendo a criterios objetivos y comunes a todos los centros al igual que se hace en el resto de los niveles educativos del sistema

y por último se ha conseguido una importante optimización de los recursos públicos existentes gracias a la cual se posibilita el esfuerzo de otros programas y proyectos de carácter estratégico en nuestro sistema educativo sorprendente el calificativo de pobre gestión

no baso mi información en recortes de prensa en la interpelación anterior

lo basa en documentos de los sindicatos comisiones obreras y ela que no son precisamente

documentos de claustros de profesores de centros de epa con los que me reúno con los que me he reunido no son recortes de prensa y casualmente usted

resulta que cuando los sindicatos los profesores los directores se ponen de acuerdo en criticar su gestión entonces resulta que están equivocados oiga mire

la realidad es que ustedes no reciben a los representantes de los centros no es verdad no no les llamaron y si les están pidiendo reuniones y no les reciben mire

de enseñanza de personas adultas convierten van a convertir si no rectifican

en centros dirigidos prácticamente en exclusiva a la obtención

o las pruebas de acceso a ciclos y a la universidad los quieren reducir a eso y los centros

niegan la posibilidad de la educación permanente en las áreas instrumentales y básicas

se podrá asistir a esos centros según su nueva normativa qué pasa con las personas que necesitan adquirir

competencias que hoy se consideran básicas y que no lo eran cuando esas personas cursaban sus estudios obligatorios

competencias básicas dónde queda la ley de aprendizaje

dónde queda le he dicho antes la meten ustedes en un cajón no es una responsabilidad suya cumplirla

cuando debatimos y discutimos aquella ley dónde queda el impulso de una oferta global de aprendizaje para las personas mayores que desean ampliar sus conocimientos su formación dónde queda eso en sus directrices artículo cuatro de la ley que aprobó esta cámara ustedes no han explicado cuál es su proyecto en este campo aplican recortes señora uriarte

denunciando los recortes en relación con la educación de adultos

no tienen un programa para esos centros se están limitando las posibilidades de muchos alumnos que se encuentran en zonas de exclusión social y laboral justo a esos a los que en peores condiciones están en este momento ustedes les limitan el acceso

con los responsables de los centros cambian los criterios de acceso y los ratios pero es que usted me ha dado los datos al revés cómo me puede decir que lo que han decidido es reducir los mínimos de grupo de diecisiete a hamar pero si lo que han hecho en el grupo uno es subir los criterios de diez a doce

pero oiga entonces será que están mintiendo los directores de los centros y los sindicatos porque le aseguro que yo no estoy hablando de informes periodísticos

si se han aprobado documentos en los claustros de los centros en el centro de epa de álava

si ha habido reuniones del claustro con documentos concretos dirigidos a su departamento por favor con estos datos le pongo otro ejemplo de castellano para inmigrantes en álava

de cincuenta y nueve grupos a seis horas lo van a dejar en veintinueve grupos a cuatro horas dígame cómo se come eso dejan a cientos de personas fuera sin plaza

comprobarlo con los propios responsables del centro van a dejar a la gente fuera en la calle

cambian las reglas del juego a mitad del partido recortan también además las posibilidades de los pueblos

y además para colmo restringen además la atención a las personas con educación especial que usted tiene que rectificar y desde aquí porque no me queda tiempo lo que le pido es que retire las resoluciones que ha presentado el gobierno en esta materia que abra un diálogo con los responsables de esos centros y que a partir del próximo curso rehaga una nueva rpt
de acuerdo a las necesidades reales de esos centros nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

no es que haya que abrirlo está abierto es continuo es continuo tanto con los centros

como le he comentado antes había con todas las resoluciones los borradores que se remiten las alegaciones que se reciben se contestan hay un calendario de trabajo

siete doce de abril se envía a los centros y sindicatos la propuesta nueve de mayo fecha límite de sugerencias doce diecisiete de mayo reuniones con los sindicatos

junio resolución de alegaciones y a partir de ahí seguimos hablando con los centros y con los sindicatos es decir el diálogo está abierto

se pretende y qué es lo que realmente está ocurriendo gobernu honek hezkuntzaren alde egin du esparru guztietan

además quiero recalcar que la totalidad de los recursos resultantes de la aplicación de esta normativa

se destinará a reforzar en forma de crédito horario los programas estratégicos del ámbito educativo entre otros se van a reforzar los siguientes programas y proyectos la educación trilingüe y plurilingüe la coeducación y prevención de la violencia de género la incorporación de las tecnologías en sare hezkuntza gelan la iniciativa compartiendo buenas prácticas y el programa hamaika esku

distintos a los establecidos anteriormente y se les ha ofrecido los créditos horarios

así como la realización de un proyecto de investigación sobre el impacto de aprendizaje de una segunda lengua en la tercera edad para estos proyectos se han dedicado créditos horarios equivalentes a cinco profesores o profesoras adicionales en dicho centros para esto hace falta hablar para esto hace falta estar con ellos y eso es lo que quiero decir hemos hablado con toda la gente y sabemos lo que estamos haciendo o sea no estamos hablando

me parece que es una descalificación gratuita o sea estamos desviando el foco de atención

hasta ahora no había un control exacto de la matrícula los centros hacían dentro de una resolución porque nosotros no hemos cambiado los límites

se han adecuado y además todo el mundo ha sido acordado con los centros es decir no es que de repente hayamos impuesto una resolución se ha recogido lo que había en las resoluciones anteriores

ordenar para que sean efectivos los medios que tenemos y que no se utilicen de mala manera simplemente es lo que se ha hecho qué ocurre pues bueno que muchas veces cuando a alguien le dicen que se tiene que ordenar que no se pueden seguir haciendo las cosas como se venían haciendo pues por lo visto le cuesta acostumbrarse realmente al nuevo orden

poner las cosas bien y hacer las cosas con orden no está bien visto no sé no sé lo que usted piensa pero me parece que estamos

consejera hoy le hago una pregunta en forma de interpelación muy concreta

su competencia de gestión de los archivos históricos de titularidad

especialmente en el ámbito de la cultura el gobierno vasco recibe una competencia se deshaga de ella transfiriendo esa competencia a las diputaciones forales se recibió en el dos mil once el convenio se hizo en el dos mil doce y está ejerciendo

su departamento en plenitud esta competencia de archivos

como instrumento de la política archivística del gobierno porque el gobierno tiene

una política de patrimonio una política de archivos y en esa política los archivos históricos provinciales son

de la comunidad por una vez en cultura tenga un instrumento para poder aplicar directamente su política en este caso

no suele ocurrir normalmente son las bibliotecas los museos propiedad competencia propiedad

en muchos casos el gobierno no tiene un museo propio no tiene una biblioteca propia físicamente ni yo pretendo que la tenga es decir siempre para ordenar la actuación del gobierno hay que partir de lo que se tiene pero con un criterio

locales que ejercen una función por razones históricas es de ellos pero sí hay un gobierno vasco que con visión de país debería en todos estos casos una política que permita que haya unos elementos comunes que además se garantice que sean efectivos en la orientación de una política cultural arbitrada

visión de país en el caso concreto de los archivos históricos provinciales afortunadamente ha llegado la competencia y tiene físicamente

unos edificios con unos contenidos con un personal y con una dotación económica para hacer una política

de país la única explicación que encuentro para que quieran pasar a las diputaciones forales cuando la tienen cuando cualquier gobierno y eso ha ocurrido en todas las comunidades utiliza esa competencia es

que no puedo no podemos los socialistas compartir desde esa perspectiva que están aplicando que es desmembrar una competencia que tienen

forales y eso porque tiene algunos problemas no es solo que es fundamental que pierda un instrumento nuclear para hacer su política el gobierno es que además

esos archivos históricos provinciales no estarían en ninguna red que los pusiera en un trabajo común continuado porque tenemos ejemplos ya en euskadi ahora mismo por ejemplo las bibliotecas

tenemos una red vasca de bibliotecas y el gobierno trata de ordenar y colaborar en una

que las de las diputaciones forales no están porque están o no si quieren

de los ayuntamientos bilbao san sebastian y santurtzi no están porque están si quieren

no tiene instrumentos para aplicar directamente una política cultural al menos en criterios básicos en todo euskadi y si hubiera una coordinación buena eficaz que resultara efectiva

eso sería admisible pero es que la práctica indica por eso le estoy poniendo estos ejemplos que las diputaciones hacen su política en su territorio y se olvidan del gobierno

en los organismos de coordinación de la administración de la comunidad autónoma en el consejo de museos en el de patrimonio en todos los consejos que tenemos

eudel participan las diputaciones a parte de otros agentes el gobierno trata de coordinar de tutelar de impulsar de dar unas directrices

que eso se hace en el caso de las diputaciones es decir el gobierno acoge a aquellos

sobre los que no tiene una competencia para coordinar pero en los órganos de las diputaciones no está el gobierno o de los ayuntamientos

deberíamos de ir reorientando eso para que haya unos mínimos comunes en todas las políticas pero por lo menos cuando se tiene el instrumento porque hay una transferencia que lo permite no se deshaga de ella

la perspectiva de país tenga una orientación de política museística

de que no estarían en red porque la práctica lo indica tampoco podrían contribuir a la mejora del funcionamiento de la administración porque ya no estarían

se podría ahora que tenemos estos archivos que tenemos el archivo central de la administración en gamarra el archivo histórico de euskadi en bilbao tenemos

se podría hacer una gestión integral de documentos por ejemplo por parte de su departamento que yo le aseguro que me imagino que cualquier consejero o consejera en su caso

un sistema integral de aquello que dependa de mí y no tiene esa ambición ni siquiera política desmembra el sistema

no van a tener esa coordinación fíjese además como no será

tampoco van a cumplir una función que hoy legitima a los archivos digo hoy en esta época y es su capacidad para divulgar la información en una época en la que hablamos de transparencia de acceso y fácil y directo de los ciudadanos a los documentos precisamente los documentos históricos los protocolos

todo lo que está en esos archivos al desmembrarse va a dificultar que los ciudadanos accedan a ese conocimiento

a uno de los centros de una diputación o de otra pero es el gobierno vasco el que tiene la mayor potencialidad para mediante sistemas informáticos mediante todos los recursos que tienen los distintos departamentos

y de forma más universal todo el contenido de esos

a los ciudadanos por lo tanto no acabo de entender espero su respuesta por qué un gobierno que tiene una competencia

cuando eso supone un perjuicio para la práctica para el funcionamiento de esos archivos para el acceso de los ciudadanos y para la visión de país
que todo gobierno debiera de tener gracias eskerrik asko reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria